sailburu jauna legebiltzarkideok arratsalde on denoi señora ubera los socialistas vascos compartimos con usted la preocupación por la que ha traído hoy

en su iniciativa como digo compartimos el rechazo expreso al real decreto dieciséis barra dos mil doce porque creemos que lesiona el derecho a la salud universal

no va a solucionar ni la atención sanitaria ni desde luego la crisis económica ni la recesión económica mundial porque la asistencia sanitaria por mucho que algunos se empeñen

en la que no se han atendido las competencias sanitarias propias de euskadi compartimos la necesidad de adoptar cuantas medidas estén a nuestro alcance

por la aplicación de este repago pero no creemos que haga falta una nueva ley que lo impida no creemos que sea necesaria ni creemos que se consiga este objetivo que compartimos empezando por lo último que hoy promoviéramos aquí hacer una ley

no va a solucionar el problema que miles de ciudadanos vascos tendrán el lunes no sería efectivo para garantizar ese derecho además están en este momento en estudio en el tribunal constitucional

en contra de este repago no se ha resuelto el fondo del asunto y ya el constitucional nos dio la razón en la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles

sobre el fondo quedó en suspenso la decisión del gobierno socialista de no aplicar

el grupo proponente que para otras cuestiones se ha amoldado bien a los ritmos judiciales debe asumir también esta realidad hacer una ley de insumisión no es una solución es un nuevo conflicto y nosotros no estamos en esta cámara para generar conflictos resolver problemas de ciudadanos lo que planteamos pues no es una nueva ley el derecho a la salud universal a la protección de la salud

y las competencias propias y el modelo vasco para desarrollar estos derechos

por tanto tenemos un marco legal tanto en el ámbito estatal como en el de euskadi que ampara estos derechos lo que nosotros proponemos es que desarrollemos todos los instrumentos

inmediata porque se puede lo que va a ocurrir a partir del lunes

que un solo ciudadano deje de comprar seis barras de pan para poder comprar su anticoagulante o al contrario que un solo ciudadano

que renunciar a un regulador del corazón para que no falte en la mesa el pan de sus hijos o nietos y esto no es populismo es una

hace seis días en esta cámara el consejero de salud una forma insultante de echar balones fuera sobre responsabilizar de garantizar los derechos de los usuarios a la sanidad

el grupo parlamentario socialista insiste en lo mismo en lo que venimos diciendo meses y meses hay que articular medidas inmediatas que impidan que nadie deba renunciar a los medicamentos que necesite aunque solo hubiera una persona en esa situación

por eso los socialistas hemos ofrecido nuestro apoyo para articular medidas creemos que se puede hacer sin necesitar cambios legales creemos que solo hace falta voluntad política y trabajo del gobierno para planificarlas también creemos que el gobierno no supo aprovechar el margen de tiempo que le concedió la actuación de oposición activa al repago que emprendió el ejecutivo de patxi lópez debió aprovechar los seis meses

por ejemplo el actual consejero pero habiendo voluntad de cambios se acaban los reproches miles de personas quieren tener hoy una respuesta nuestra de aquellos que les representamos

por eso planteamos que además de reiterar el rechazo tantas veces reiterado en esta cámara además renovar nuestro compromiso con el derecho a la salud

y además de declaraciones voluntaristas que garanticemos ese derecho y lo hagamos con los instrumentos

con el grupo que apoya al gobierno por el que comprometemos al gobierno a asumir las compensaciones al copago para todas aquellas personas con ingresos menores

y que se haga a la mayor brevedad y con efectos desde el inicio del copago el gobierno tiene los datos las farmacias tienen los datos fiscales falta solo decidir por el gobierno el mecanismo por el que se va a compensar

el pse va a estar vigilante en el cumplimiento de esta resolución por ello no vamos a retirar

interpelación que realizamos el viernes pasado al señor consejero y que veremos

para seguir vigilando el cumplimiento de esta resolución nada más que agradecer al gobierno y al grupo parlamentario que ha

en su momento nada más y muchas gracias eskerrik asko roncal

el decreto ley dieciséis barra dos mil doce de veinte de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones

manteniendo siempre la prestación de la salud de los ciudadanos

es necesario articular un sistema de financiación que otorgará estabilidad a nuestra sanidad la actual situación de crisis económica ha dejado en evidencia las debilidades y carencias de nuestro sistema de salud

en el partido popular queremos blindar la sanidad pública de los efectos de la crisis económica para que siga siendo el pilar del estado de bienestar sabemos además que la sanidad

que la sanidad como digo es el servicio público más valorado por los ciudadanos y porque todos sabemos que en españa tenemos uno de los mejores sistemas de salud y como todos ustedes comprenderán desde el partido popular queremos mantenerlo asegurar su futuro

porque entre otras cuestiones tenemos la responsabilidad de gobernar en el gobierno de españa las medidas adoptadas se encuadran en un ambicioso plan que garantiza la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema y que

y que lo que persigue es generar confianza en nuestros pacientes señorías se garantiza el actual modelo sanitario recogido en la ley general de sanidad hay cambio de modelo se mejoran los procedimientos para el acceso a la asistencia sanitaria evitando incertidumbres inseguridades abusos que también existían y estaban detectados y ahí está

del tribunal de cuentas como creemos que el principio que sustenta la reforma emprendida y las medidas es dar una atención sanitaria de calidad con una gestión eficiente de los recursos existenciales este es el contenido de la enmienda presentada por el partido popular a la iniciativa original del grupo eh bildu

hoy no ha utilizado este término señora roncal seguramente porque está un poquito más satisfecha y

en la interpelación del pasado viernes por lo menos ha utilizado el término copago si tenemos que hablar de copago o de la participación de los usuarios o mejor dicho de la participación de los usuarios

es evidente que una de las asignaturas pendientes de nuestro sistema de salud era diseñar una estrategia definida en farmacia ya que no en vano

del gasto sanitario conviene recordar otra vez que en españa

pese a no ser el país más poblado ni el más enfermo

consumidores de medicamentos afirmación además corroborada por distintos consejeros de sanidad

las declaraciones del señor bengoa al respecto y no una vez sino varias veces se han llegado a acumular

toneladas de envases que han ido a la sigre es decir a la basura

cada año cuarenta y cinco millónes de envases recetados sin abrir esos son los datos señorías

el anterior sistema de copago generaba claras injusticias que el nuevo sistema corrige como que los parados sin prestación los parados de larga duración tenían que abonar

independientemente de su renta estaban todos en la misma situación quería puntualizar también varias cuestiones en relación

de participación de los usuarios porque hay que recordar que aquí ya se pagaban las medicinas o ya pagábamos las medicinas incluso los parados

con el gobierno del señor zapatero no es un copago sanitario

de la unión europea en donde sí hay un copago sanitario por recibir atención médica atención primaria hacerse pruebas diagnósticas atención especializada dos ejemplos en austria en la atención primaria se paga tres coma sesenta y tres euros por episodio de enfermedad

un país en el que nos miramos mucho diez euros por la primera visita en cada trimestre estoy hablando de la primera visita podría poner más ejemplos pero bueno

resaltar hoy aquí con los nuevos criterios que se tienen en cuenta

establecido un nuevo sistema en relación a tres criterios a la edad

se ha arbitrado sin duda un sistema más justo y más equitativo

y los que menos tienen o no aportan nada o aportan mucho menos y encima hay colectivos exentos

de la semana pasada hablaba de las bondades de este decreto al hablar de los colectivos que estaban exentos usted

contempladas en la normativa específica los perceptores de rgi o de pensiones no contributivas personas de larga duración parados de larga duración

las personas que antes pagaban ese cuarenta por ciento y ahora no pagan personas en tratamiento derivada de accidente y enfermedad profesional personas

qué les parece les parece mal que los parados sin prestación ahora estén exentos o les parece mejor que paguen el cuarenta por ciento de sus medicinas como tenían que hacerlo con el gobierno

les parece mal que los pensionistas paguen en función de la renta o les parece mejor que estén todos en la misma situación como sucedía con el gobierno del señor zapatero

prescripción de las dosis adecuadas en cada tratamiento se ha impulsado también la revisión de precios se ha impulsado también

de la factura farmacéutica los datos están ahí

el ahorro en farmacias supera los ciento nueve millónes de euros en mayo de dos mil trece en los últimos doce meses desde la entrada en vigor de las nuevas medidas se han ahorrado más de mil setecientos cincuenta y dos millónes de euros es el ahorro interanual

reducción del doce coma siete por ciento en relación al mismo mes del año anterior tendencia como digo a la baja

salvo en una comunidad autónoma salvo en euskadi el país vasco es la única comunidad autónoma

el gasto en recetas con un incremento del dos coma dos por ciento respecto al mes anterior aquí se pueden ver todas las comunidades cómo en todas desciende

por ciento todos los consejeros han señalado que es un sistema que no ha generado problemas también ahí están los testimonios de los colegios farmacéuticos

claramente que había un consumo innecesario e incluso un derroche

sin duda un sistema más equitativo y más justo señorías decía el consejero además la semana pasada que con independencia de visiones apocalípticas

manera continua la mayoría de las prescripciones corresponden a analgésicos antiinflamatorios y antibióticos tampoco parece que el copago vaya a desequilibrar a las cuentas de aquellos activos o pensionistas con rentas superiores a cien mil euros

con la consideración de medicamentos de aportación reducida los llamados punto negro o cícero lo que significa esos medicamentos que tienen que aportar

que tienen que pagar solo el diez por ciento con la máxima que todos sabemos que se recoge en el decreto por lo tanto un sistema mucho más equitativo mucho más justo que va a poner freno al derroche y al gasto innecesario de medicamentos

toneladas de medicamentos que han caducado en los hogares familiares respecto a la iniciativa inicial el partido popular va a mantener su enmienda creo que lo que pide el partido popular

del sistema y aquí también y que se haga un

asistenciales para dar una asistencia sanitaria de calidad y respecto a la enmienda y al acuerdo acordado entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista que creo que hoy no tocaba señora roncal pero bueno ya sabremos porque tocaba hoy y no tocaba más tarde

no compartimos la necesidad de que las personas en la comunidad autónoma de euskadi tengan que pagar más para que osakidetza funcione mejor o para avanzar su sostenibilidad

nos oponemos a la invasión de competencias en materia sanitaria de forma unilateral por parte del gobierno de españa y apoyamos al gobierno vasco para que siga defendiendo nuestro marco competencial en materia sanitaria apoyamos el recurso inconstitucional interpuesto por el anterior ejecutivo

a que agote todos los cauces legales existentes para la defensa de nuestro autogobierno

a las medidas impuestas por el real decreto ley dieciséis barra dos mil doce

nuestro grupo también ya planteó la necesidad de que en previsión de que el gobierno vasco se viera obligado a aplicar el copago en la prestación farmacéutica estudiara sus repercusiones económicas

y ello al objeto de conocer las posibles alternativas que pudiera haber para paliar y corregir esos efectos negativos

gracias presidenta buenas tardes a todas y a todos señores consejeros señor

nosotros nos hemos posicionado siempre en contra de los recortes sociales impulsados por el gobierno vasco y también

el gobierno de españa nos hemos posicionado siempre en contra de los recortes sociales impulsados desde el gobierno de españa tanto los impulsados por este gobierno como por los impulsados por el gobierno anterior de españa nos hemos posicionado en contra de todos los recortes y los ha habido muchos en los últimos tiempos recortes educativos recortes sanitarios

nos hemos posicionado en contra de la bajada del sueldo de los funcionarios de la bajada de las pensiones o de la supresión de la paga extra de dos mil doce a los funcionarios y en contra de todas las reformas laborales que este gobierno y el anterior han impulsado en los últimos años nos hemos

de todas aquellas medidas que hemos considerado que eran injustas e innecesarias y que perjudicaban los intereses de los ciudadanos y lo hemos hecho aquí y lo hemos hecho también en el congreso de los diputados y hemos planteado políticas

de recortes nos hemos posicionado en contra de la implantación del copago farmacéutico que no es copago sino repago y hemos dicho que es una medida innecesaria

muy negativos en el corto y en el medio plazo como todos los expertos han explicado por activa y por pasiva lo que ocurre es que es una medida impulsada

cumplimiento por lo que yo creo que básicamente podemos hacer lo siguiente proponer medidas alternativas y criticarlo en el congreso de los diputados

este gobierno de españa o cambiar las políticas impulsadas por este gobierno de españa creo que esto es lo que podemos hacer no veíamos y vemos la creación de un fondo de compensación aquí se plantean

me pregunto si ustedes plantearán también medidas compensatorias para compensar la congelación o la reducción de las pensiones o para compensar la bajada del sueldo

y me pregunto quién impulsa medidas de compensación para compensar los recortes de este gobierno vasco y me pregunto para qué distribuimos

cada administración puede crear o impulsar sus propias medidas compensatorias que compensen los recortes que otras administraciones de rango superior

crearán los ayuntamientos que puedan fondos que compensen los recortes del gobierno central

las diputaciones forales nosotros no lo vemos por otro lado

de dónde va a recortar dónde va a recortar cuáles son esas medidas concretas que se van a impulsar cuáles son esas medidas compensatorias que ahí se citan que se van a impulsar y a costa de quién y a costa de qué exactamente cuáles son esos recortes nuevos que se van a impulsar para poder aplicar estas medidas

esas alternativas creo que este tipo de medidas son un paso que ahonda en las diferencias existentes en españa y nosotros por lo tanto no podemos compartirlas por otro lado no podemos olvidar que es gracias al concierto económico y al cupo vasco y a la sobrefinanciación que provocan tanto el concierto económico como el cupo vasco por lo que nosotros

incluso a costa de los restantes ciudadanos españoles lo cual tampoco nos parece ni muy igualitario ni muy justo ni muy solidario por lo tanto no lo compartimos y nos compartimos en todo caso la filosofía política que se ha implantado en los últimos tiempos en españa que es el sálvese quien pueda autonómico no lo vemos y no lo compartimos

portavoz socialista si este tipo de medidas o semejantes o incluso fondos de compensación se han venido aplicando en los últimos meses

o si se plantea plantear este tipo de iniciativas o semejantes donde ustedes gobiernan y que pudiera usted explicarlas efectivamente cuáles han sido y si efectivamente se han aprobado por lo tanto esta es la posición política de upyd dicho esto y vista la transaccional

la votación por puntos porque efectivamente alguno de los puntos sí podría contar con nuestro voto dado que insisto nosotros nos hemos posicionado siempre

de todos los recortes y en contra también del repago farmacéutico pediría por lo tanto la votación por puntos algún punto podríamos apoyarlo
algunos otros puntos nos abstendríamos ante ellos gracias eskerrik asko maneiro jauna

le hemos dicho que compartimos la motivación por la que han traído esta iniciativa pero también le hemos dicho que lo que urge es buscar una solución al problema de los ciudadanos pero ustedes han preferido envolverse en la pancarta y la pancarta sola no resuelve estos problemas para estar hoy aquí defendiendo sus posiciones han tenido que acatar la constitución y la ley de partidos porque es de obligado cumplimiento y no les valió la insumisión ni la rebelión ni ninguna otra cosa añadida a ustedes lo que les sirvió fue entender que el camino de la legalidad es la que permite resolver problemas

y el decreto ley dieciséis barra dos mil doce ocurre lo mismo es de obligado cumplimiento no cabe la insumisión para resolver el problema de los ciudadanos

a cuatro días de que miles de ciudadanos tengan que pagar por medicamentos que hasta ahora

prometerles una ley futura por supuesto de insumisión que iba a ser perfectamente recurrida no les va a solucionar su economía doméstica

el derecho a la salud nosotros no descartamos las reformas legales que hubiera que hacer falta para mejorar los servicios públicos y los derechos básicos de los vascos pero en este caso valoramos que por fin este parlamento

a la mayor brevedad mecanismos de compensación es una buena noticia para los ciudadanos

habían defendido hasta hoy mismo y en lugar de explicar a los ciudadanos que el parlamento sirve para esto

en aras a conseguir logros para los ciudadanos han preferido quedarse en la mera reivindicación les invito a pesar de todo que se sumen a la transacción acordada propone lo que ustedes defienden el compromiso con el derecho a la sanidad

el rechazo al copago y la aplicación de medidas compensatorias especialmente para los colectivos más vulnerables más allá de su postura maximalista ustedes también se pueden sumar a este acuerdo que ofrecer a los ciudadanos señores del pp

son falsos en los datos que se refieren al gasto farmacéutico de euskadi

solo se habla del gasto de la atención primaria el que se realiza mediante la receta a los ciudadanos por tanto esos datos

miles y miles de recetas y es el responsable del gran consumo de farmacia que hay en toda españa y por supuesto la larga mano de zapatero ha llegado al consumo farmacéutico de euskadi da la impresión no ha podido usted evitar lo siempre es el zapatero el responsable de todos los males

aunque creo que es totalmente inmovilista pero es coherente ustedes le retiraron el respaldo

precisamente por su oposición al copago y a la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles y hoy siguen en esa misma posición

y espero que sea en un tiempo no muy lejano de la poca efectividad que tiene esta medida para el ahorro porque reducir el acceso a los medicamentos es provocar

no puede creérselo nos gustaría por el contrario que tuvieran un poquito más

y que defiendan las propias competencias para hacer una política diferente en euskadi

al partido nacionalista vasco agradecer el giro cómo no

no tenemos ningún problema en sumar nuestros votos a los suyos precisamente en ocasiones como estas

se empeñe en criticar que les quede claro los socialistas no estamos aquí para oponernos por oponernos a lo que plantee el gobierno nosotros no estamos en este parlamento para hacer lo mismo que hicieron ustedes cuando no gobernaban hemos dado

de nuestro compromiso en impedir medidas lesivas para los ciudadanos

en la que estamos blindando los servicios públicos y para ello muchas veces hay que desnudar la actuación del gobierno si nos parece timorata o escasa o dañina lo denunciaremos

tendrán ustedes nuestro apoyo así que nada más que agradecer la voluntad

y que los ciudadanos tengan la sensación y además comprendan que las decisiones de este parlamento sirven para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos

señora presidenta gracias voy a empezar con usted señora roncal porque no lo puedo evitar aunque luego vuelva

en el partido popular en la defensa por ejemplo del concierto económico desde luego aquí lo que no nos puede dar lecciones el partido socialista y en este caso el partido socialista de euskadi es lecciones de defensa de autogobierno donde está pidiendo una revisión del cupo y lecciones de coherencia y menos a nivel nacional

lo que dice como uno dice que se suprime el señor pera navarro dice

rubalcaba como está poco orden puede poner y respecto a las elecciones recordarle muy claramente por qué el señor basagoiti dijo lo que dijo porque al final teníamos un lehendakari que no estaba gobernando y no estaba liderando el gobierno vasco que era lo que tenía

si ustedes hubieran seguido gobernando y no hubieran convocado las elecciones de forma anticipada que las convocaron por los que todos sabemos porque iban a tener que presentar un presupuesto con unos ajustes de mil doscientos millónes de euros pues hubieran tenido que aplicar sin ningún

de inconveniente el copago o como usted le gusta decir el repago que no voy a utilizar yo ese término como también aplicaron la rebaja del sueldo de los funcionarios en el cinco por ciento o sea quiero decir que lo hubieran aplicado es más

ocurrido compensar a los colectivos más vulnerables que aquí todos

la cuantía de la renta de garantía de ingresos en un siete por ciento fue lo primero que hicieron ahí están los colectivos más vulnerables

los datos en mayo ciento nueve millónes de euros de ahorro desde julio ciento veinticinco millónes

y todas las comunidades autónomas han disminuido el gasto farmacéutico datos señora del ministerio son datos publicados por un medio de comunicación que no veo que el partido socialista

en esta comunidad autónoma haya salido a desmentir

de dieciséis a veinte millónes de euros que aparte de que en la interpelación del viernes pasado nos decía

cómo afecta esta medida a las personas con menos recursos primero iban hacer eso

no hablan de eso no hablan de primero ver cómo afecta y evaluar cómo afecta esta medida concreta a las personas con menos recursos al grupo de pensionistas con rentas anuales de menos de dieciocho mil euros ya en la enmienda de transacción

el alcance de este acuerdo sin ninguna duda hablan de medidas de compensación para todas aquellas

es decir usted en la intervención del viernes pasado hablaba de

transa ya este texto concreto que era la reivindicación del partido socialista ahora que está en la oposición desde luego si hubiera estado en el gobierno no hubiera planteado nada semejante

otras cuestiones en cualquier caso también nosotros solicitamos la votación por puntos porque no vamos a votar

de este punto pero vamos a mantener una posición de coherencia como bien ha dicho la señora roncal y también le tengo que decir que el copago no es una cuestión que se la haya inventado el partido popular pero si ya la señora pajín

que el copago sanitario simbólico aquel que sirve para garantizar el uso racional de los servicios cobrando una pequeña cantidad de dinero a los ciudadanos cada vez que acuden a la consulta del médico serviría para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud la señora pajín cuando era ministra de sanidad en el año dos mil diez la señora trinidad jiménez que también fue ministra de sanidad

en los servicios sanitarios hablaba directamente no hablaba de copago farmacéutico hablaba directamente de establecer copago sanitario en los servicios farmacéuticos lo que existe en alemania en austria y señora roncal usted de conoce de primera mano

el señor jauregi decía que habría que incorporar copagos en la sanidad
si se quiere que siga siendo universal mesedez isiltasuna no sé les debe de causar mucha

dirigente cualificado del partido socialista en euskadi que había que incorporar copagos en sanidad si se quiere que siga siendo universal y avanzada

es que el anterior consejero de sanidad inauguró la legislatura en una entrevista

en función de los ingresos de los pacientes lo decía el señor bengoa que lo que hay que hacer es estudiar si después de poner en marcha todas

se necesitaría implantar un sistema de cofinanciación de los servicios sanitarios de momento

que la decisión tenía que ser absolutamente nacional seguramente porque igual el señor bengoa

más claras que algunos miembros del partido socialista y cuando digo que los pensionistas con rentas altas deben pagar los medicamentos estoy hablando de asegurar la progresividad igual que se hace con las políticas fiscales y voy acabando señora presidenta decía hay pensionistas que cobran más de dos mil quinientos euros al mes y no cotizan

estén en la misma situación que se tenga en cuenta las rentas y que los parados de larga
duración sin prestación que con el gobierno del señor zapatero pagaban el cuarenta por ciento ahora no paguen eskerrik asko garrido

esaten du medidas sobre la prestación farmacéutica eta

esaten du la aportación del usuario será proporcional al nivel de renta se actualizará como máximo anualmente eta hamalaugarrena atalean

podrá tratar datos sobrantes en los ficheros de las entidades gestoras de la seguridad social

entidades que colaboran con las mismas que resulten imprescindibles para determinar la cuantía de la aportación de los beneficiarios en la prestación farmacéutica

la administración competente en materia tributaria podrá comunicar

los datos que resulten necesarios para determinar el nivel de renta requerido

a las administraciones sanitarias competentes kasu honetan jaurlaritza izango zen

el dato relativo al nivel de aportación que corresponde a cada usuario en ningún caso dicha información incluirá el dato de la cuantía concreta de las rentas

modificación de la ley cincuenta y ocho barra dos mil tres general tributaria horretan esaten du la letra cien del apartado uno del artículo noventa y cinco

queda modificada en los siguientes términos los datos

obtenidos por la administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado

o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros eta salbuespen batzuk ezartzen ditu salvo que la cesión tenga por objeto

en las prestaciones del sistema nacional de salud hau da

muchas gracias señora presidenta señorías de manera breve traemos una preocupación

a esta cámara en relación con los centros educativos de nuestra comunidad que están en este momento acogiendo un alto porcentaje de alumnos inmigrantes y por eso además tienen que responder a unos retos muy concretos en este momento además de crisis económica que afecta a los centros y también a las familias

niños cursan sus estudios en esos centros especialmente afectados en este caso nosotros queremos hoy referirnos

determinadas zonas de nuestra comunidad la distribución

inmigrante entre redes es proporcional al conjunto del alumnado que escolarizan así en determinadas zonas de gipuzkoa

y de bizkaia efectivamente hay un equilibrio

soportan determinadas redes pero efectivamente nosotros queremos hoy referirnos a aquellos centros que especialmente soportan unpeso determinante

centros públicos y concertados que tienen tasas del setenta del sesenta hasta del ochenta por ciento incluso superiores

inmigrantes el consejo escolar de euskadi en sus informes sobre la situación de la enseñanza en la comunidad autónoma del país vasco manifestó

en diversas ocasiones la necesidad de asegurar para estos centros de un perfil socioeconómico más bajo y además lo hacía

o centros concertados independientemente de su titularidad los recursos debíamos

asegurar los recursos suficientes los recursos idóneos adecuados que les permitiesen obtener unos mayores niveles de éxito escolar

manifiesta en sus propios informes que los centros con un bajo y sé que el índice

del alumnado con un alto número de inmigrantes necesitan más recursos y que además estos recursos les tenían que llegar

del refuerzo educativo independientemente de su titularidad nosotros queremos hacer especial referencia a las situaciones que se están viviendo en el centro de vitoria en el casco viejo de bilbao y en determinados municipios del país vasco centros públicos pero también

de congregaciones religiosas que están en este momento soportando un peso muy importante de alumnado inmigrante y que están viviendo condiciones muy difíciles que les hacen muy complicado continuar con su tarea educativa

religiosos como el de la ronda la presentación de maría en el casco viejo de bilbao de las hijas de la cruz de vitoria la milagrosa de barakaldo ángeles custodios también en bilbao o santa maría de artagán también en bilbao o san pedro apóstol en bilbao ibaigane

o centros de san sebastián como la presentación de maría o san josé

muchos años han estado manteniendo un compromiso firme educando en la diversidad atendiendo a las familias con mayores problemas en

degradadas que han atendido con especial interés a los alumnos inmigrantes y que se ven en este momento

que necesitan de una atención específica y que muchas veces han estado fuera del foco porque efectivamente siempre se ha trasladado la sensación de que era la red pública la única que asumía el peso de la atención al alumnado inmigrante tenemos que reconocer que kristau eskola y en concreto

han y vienen realizando desde hace muchísimo tiempo una labor enormemente importante que creo que debemos reconocer y que la administración educativa

nosotros queremos desterrar la diferencia entre titulares a la hora de abordar la respuesta específica

nosotros lo que queremos es traer aquí esta preocupación y tratar de conseguir un compromiso firme del departamento de educación está hoy aquí también la consejera creemos que es preciso alcanzar y creo que en esto a la vista de las enmiendas que han presentado los diferentes grupos estamos todos de acuerdo creo que es posible alcanzar un compromiso que además de seguir

los programas que ya tiene en este momento en marcha la administración educativa en relación con la atención a la diversidad en relación con el refuerzo educativo el refuerzo de los profesores hay que insistir en la formación del profesorado que atiende al alumnado inmigrante hay que insistir en los programas de refuerzos pero hay que insistir también

en programas específicos especialmente diseñados para aquellos centros con esas enormes tasas

específicos nosotros creemos que más allá del profesorado de refuerzo de que se les incorpore a programas de atención a la diversidad necesitan más recursos unos programas específicos

sus enseñanzas en esos centros alcanzar unos mínimos escolares unos mínimos resultados yo creo que todos debemos defender un éxito escolar

saihesteko y es en la consecución de ese fin por lo que el gobierno está trabajando

y fortalecimiento lingüístico den sus frutos existen al respecto varios planes elaborados por el gobierno anterior

por un lado tenemos el plan de atención educativa al alumnado inmigrante en el marco de la escuela inclusiva e intercultural

y el plan estratégico de atención a la diversidad en el marco de una escuela inclusiva dos mil doce dos mil dieciséis ambos planes reflejan un análisis actual de la situación y recogen medidas a adoptar medidas estas en los extremos reflejados en la enmienda de transacción que hemos firmado con euskal herria bildu

pero que está muy concentrada en lugares muy específicos aunque también establece medidas más generales para la consecución de una escuela vasca más inclusiva

y señor oyarzábal no ha sido posible que la firma de su grupo quede reflejada en el texto transado una verdadera sobre todo cuando los grupos partícipes en esta proposición no de ley vamos todos en la misma sintonía que es el apoyo la mejora y la lucha

aseguren los recursos necesarios que su caso requiere es por ello que

señor oyarzábal ya estamos en ese más allá que usted menciona usted nos pone casi casi en la antigüedad con lo que usted plantea hoy es decir llevamos años

y con decisión por todo el alumnado inmigrante o extranjero que también esa nomenclatura se utiliza en eustat

y ello por varias razones primero por una cuestión de justicia individual es decir toda persona se merece una atención educativa conforme

segundo por una cuestión de cohesión social y en eso

y tercero por una cuestión de progreso de país porque no podemos desaprovechar ningún talento ninguno ni el propio ni el que ha venido por lo tanto esas son las razones por las cuales venimos trabajando al margen de la titularidad

el que haya mencionado dos programas de gran importancia para hacerlo uno el plan estratégico de atención a la diversidad

de las altas capacidades intelectuales pasando absolutamente por toda la gama

por aquellas personas que tienen una historia que les impide desarrollar destrezas con la celeridad que merecen

ese gran plan de atención estratégico a la diversidad tiene además otros planes que vienen a concretarlo y es efectivamente que aquí se ha mencionado el plan de atención al alumnado extranjero donde efectivamente se empieza por hacer un ejercicio importantísimo de participación con el centro de participación entre el centro la administración educativa a través de los berritzegunes inspección servicios y es el propio centro

una actitud proactiva con respecto a la

que integra por lo tanto empezamos por el propio proyecto de centro un proyecto global esto señorías que debiera

tenemos varios escritos de disconformidad de algunos centros que se han enterado de la resolución

centros que escolarizan precisamente ese tipo de población me consta la buena voluntad del departamento en esta materia pero creo que no ha habido suficiente comprensión de cómo

este asunto porque si el propio centro no se compromete si no sale del propio centro el proyecto que quiere tener para integrar a su población entonces

solo servirá para poco no se trata solamente de más cupo de profesorado se trata de atinar identificando los perfiles que son necesarios y eso sale obviamente de un proyecto participado entre la administración el centro en este momento tenemos aproximadamente quince mil alumnos y alumnas extranjeros en el sistema educativo vasco

están escolarizados en la educación pública por tanto la educación pública hace un esfuerzo equivalente a algo mayor a los dos tercios de esfuerzos si lo midiéramos en esos términos

como ha dicho la señora arrondo aquí el sesenta y seis por ciento de la población extranjera sino que en ese sesenta y seis por ciento

al ochenta y dos por ciento de la población total procedente de áfrica y claro esto obviamente señorías supone un esfuerzo adicional

en las distintas costumbres en las distintas culturas por tanto aunque dentro de esa escolarización de alumnado inmigrante tenemos un cuarenta y siete por ciento

esta población realmente no requiere esfuerzo adicional puede tener un desfase

lo que realmente requiere un esfuerzo adicional es la población rumana porque el veintidós por ciento que procede de europa fundamentalmente son rumanos y los que

áfrica veinte por ciento quince por ciento del cual proceden del norte de áfrica y utilizan lenguas distintas

precisamente se necesitan profesores de refuerzo lingüístico para esto se necesitan dinamizadores culturales para esto se necesitan proyectos globales de centro etcétera pero la

ha de ser aquella que requiere el centro por lo tanto nuestro universo de trabajo no es la titularidad señor oyarzabal yo le reconozco a usted y estaba conforme con la iniciativa que usted ha puesto y desde luego con la transacción y yo le reconozco que naturalmente hay centros concertados que concentran población inmigrante ciertamente

pero cuando la población inmigrante se concentra se concentra por afinidad familiar por amistad porque se encuentran mucho más

escolarizar a los hijos e hijas de un investigador que viene a ikerbasque

suscitar ningún problema adicional aunque hable en inglés hable en alemán o hable en ruso no suele suscitar problema adicional suscita problema cuando los hijos e hijas son de población mucho más de estatus

tienen todo el derecho a agruparse pueden ejercer su libertad de elección para agruparse

nuestra única manera de aportar esos recursos adicionales que requiere es mirando al centro ese debe ser nuestro universo de trabajo y desde luego prestando esos recursos adicionales juntamente con el centro desde luego hay que respetar la libertad de elección de estas familias que viven entre nosotros que tienen todo el derecho de ejercer y ciertamente pues sí

este tipo de alumnado pero yo creo que debemos tener señorías en esta comunidad que trabaja

hay centros que concentran mucha población de inmigración y sin embargo no desean ser llamados guetos y puede haber centros que tienen menos concentración y sin embargo se autoconsideran guetos

que realmente desarrollemos esa sensibilidad porque hay centros que están trabajando con inmigración tienen vocación de trabajar precisamente con la

y desde luego lo están haciendo excelentemente bien dicho esto ciertamente los recursos son escasos por naturaleza siempre convendrá tener más pero no miramos señorías los recursos exclusivamente por más cupo

la adecuación con las necesidades del centro nada más y muchas gracias eskerrik asko

en que se han hecho cosas hay programas que funcionan pero hay

que referidas a los centros que concentran el mayor número de inmigrantes y las tasas más altas de la inmigración y que reciben a los alumnos con mayores dificultades familiares en sus niveles socio económicos y culturales creemos que todavía hay un recorrido que hacer yo creo que hay muchas cosas que mejorar y desde luego quería poner de manifiesto especialmente

especialmente momentos de gran dificultad y a los que tenemos que ayudar de manera específica nada más y muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna

baten kaltean es verdad que se han producido avances legislativos pero no son suficientes en la creación de una conciencia ciudadana solidaria

bisexuales y transexuales y su realidad deben participar las y los representantes políticos de forma especial y prioritaria

de las asociaciones de transexuales lesbianas y gays mediante la defensa del derecho fundamental a ser y sentirse pero también siendo capaces de elaborar con absoluta naturalidad propuestas rigurosas y sinceras que nazcan de su sensibilidad y de su sentido de la responsabilidad

y asumiendo como autocrítica las carencias y olvidos del pasado y la responsabilidad que con estas personas se tiene en la situación actual

al tiempo que sobre él se construyan políticas activas antidiscriminatorias que avancen de manera sustancial en el camino de la igualdad real

el parlamento vasco llama a todas las instituciones públicas y ciudadanía vasca en general a mostrar su adhesión a estas iniciativas a favor de la lucha por la igualdad y a desarrollar una labor proactiva en la lucha contra la homo lesbofobia

transfobia así como cualquier forma de discriminación latente en nuestra sociedad ontziolen aldeko adierazpen instituzionala

por todo ello el parlamento vasco exige a la unión europea que cualquier interpretación sobre la gestión económica y comercial

no ponga en riesgo el futuro de los mismos busque la conciliación de intereses de todas las partes

este debe ser el verdadero objetivo de todas las políticas económicas y sociales de la unión europea y adopte las decisiones en situación de igualdad con respecto

a otros precedentes como el caso de francia insta al gobierno vasco y al gobierno de españa a defender este planteamiento político con toda la fuerza y vigor

apoya las movilizaciones realizadas hasta el momento por los y las trabajadores

hiru da traslado de esta declaración a los comités de empresa de alfus fcc ámbito eta incoesa

insta al departamento de desarrollo económico y competitividad a revisar cuantos acuerdos contractuales o relación económica a modo de ayuda o subvención se mantenga con las empresas alfus fcc

y destrucción de empleo que a día de hoy se plantea eta besterik gabe gai zerrenda agortuta